presidenta señorías de nuevo upyd acude a esta cámara en un intento de utilizarla para extender la alarma extender la sospecha

concreto sin ningún dato objetivo abrir inspecciones preventivas o procedimientos preventivos por si en el pasado pudiera haber ocurrido alguna cosa

ya le advertimos en un debate anterior

algunas decisiones políticas que no íbamos a colaborar con usted en esta pretensión en utilizar esta cámara

para levantar sospechas cuando no es necesaria la utilización de esta cámara para perseguir si alguien tiene algún indicio o alguna prueba de delito ese delito

acceso a los tribunales tiene acceso a la fiscalía puede interponer denuncias ante las haciendas forales y por lo tanto

que hacen posible la investigación y la persecución del delito allí donde se produzca obviamente razonando

indicios y mediante pruebas la existencia

de esa situación y por lo tanto la fiabilidad de la denuncia

no parece que tiene estas pruebas no parece que tiene estos indicios

y por eso quiero utilizar esta cámara porque probablemente ante la debilidad de sus indicios o de sus pruebas si es que las hubiere se trata

y una cierta alarma una cierta sospecha como estamos en absoluto desacuerdo con esta utilización torticera de la cámara es por lo que

rechazarlo rechazar su propuesta como ya le habíamos advertido con anterioridad aunque después pensamos que era

el de rechazar sin más y por eso hemos presentado una enmienda de totalidad una enmienda en la que se plantean dos cosas por un lado que

o el buen hacer de las personas que han tenido responsabilidades públicas y en segundo lugar para volver a decirle que si tiene

vaya a los tribunales porque de lo contrario usted estaría colaborando con el delito

que se han podido cometer actos delictivos y simplemente se dedica a opinar sobre ellos y no

una condición política que le obliga a colaborar con la justicia

usted se convertiría en un colaborar de esos presuntos delitos por lo tanto

invitar a que cuando tenga estas cosas acuda a los cauces correspondientes y desde luego lo que no vamos a hacer

en algo que además los hechos que son más tozudos la realidad que es más tozuda que sus malas intenciones ha puesto de manifiesto y es que afortunadamente y yo reivindico

afortunadamente en euskadi a través de la participación política ha habido tres cajas que en conjunto han estado bien gestionadas

de muchas décadas que gracias a ellas se ha cubierto con una función social se ha hecho una política social se ha hecho una política pública de repartir buena parte de esa buena gestión y de esos resultados entre el conjunto de la ciudadanía

y yo quiero reivindicar ese buen hacer de las cajas porque es de justicia hacerlo y la mejor manifestación o la última manifestación o la mejor

se aprecia cual es la fortaleza de las tres cajas y de lo que las tres han sido capaces de ir poniendo en pie en la que se aprecia que

de su historia han tomado decisiones más allá

que otra en general bastante buenas para la economía vasca y para la política pública y para la política social vasca

esté en una situación mejor que la que puedan estar otros bancos solventes en el conjunto del país por lo tanto es mentira y vuelve usted aquí a mentir

aquí se haya utilizado la política para manosear el funcionamiento de las cajas para tomar decisiones equivocadas para destinar los recursos a lo que no tenía que ser o a lo que no eran

y por eso yo quiero aprovechar también esta ocasión para reivindicar el buen hacer de esas corporaciones económicas

de muchísimo tiempo y desde luego muy participadas por la política no solo por la política pero muy participadas por la política

no hayan necesitado la intervención de nadie se hayan podido valer de sus propios recursos

las decisiones que les hicieron fuertes en el pasado y que les han hecho fuertes en el presente

ese sector financiero es un sector que ha manejado casi la mayoría de los recursos del conjunto de nuestra sociedad

permanente de los ciudadanos y ciudadanas mayoritarios de esta comunidad para que pudiesen trabajar y pudiesen

el conjunto de los grupos parlamentarios excepto usted desde una posición política sensata razonable apoyen la propuesta que hemos hecho que en realidad nuestra enmienda lo único que hace es justicia con la realidad y con la verdad

y el buen hacer de las personas que han administrado las cajas vascas hasta ahora y porque creo que este parlamento le va a exigir

esa enmienda de totalidad le va a exigir a usted

de algún delito vaya a la justicia porque hoy si esto sale aprobado le va a poner tareas a usted este parlamento le va a decir dónde tiene que ir este parlamento le va a decir dónde tiene que ir cuando usted tenga algo que denunciar y que por lo tanto no trate de utilizar esta cámara para hacer la antipolítica que es lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo

la verdad es que esta es la típica iniciativa de esas demagógicas

y si votas a favor es que no sé exactamente qué es lo que pretende

yo le voy a decir que me ha sorprendido varias de las justificaciones que usted aporta porque usted nos dice que viene denunciando la politización de las cajas

que los bancos públicos cajas o bancos no estoy de acuerdo con ellos no sabía que usted era partidario de la privatización también pero bueno bienvenido al club porque le tengo que recordar a usted que

lo nombran y lo gestionan los representantes públicos elegidos por los ciudadanos y cuando a mí me parece que algo debe ser público pues es evidente que el que gobierna en ese ayuntamiento en esa diputación en el gobierno vasco o en el gobierno de españa tiene que ser responsable

de lo público pero sin lo público queda muy bien criticar a todo el mundo pero bueno

permitir si usted me lo permite es que venga usted aquí a ponerse medallas de absolutamente nada y menos de las tarjetas opacas de bankia

y menos de esas porque usted sabe yo sé y todos sabemos que en fin no se ha descubierto gracias

ni a la señora rosa díez ni a upyd ni a upyd por lo tanto

pues en fin no se ponga medallas que no le corresponden si a lo que ha venido hoy aquí es a eso me parece que va a salir usted

pero luego le tengo que decir a usted otra cosa vamos a ver usted si de verdad si de verdad quería que se investiguen

usos o malos usos de algún consejo de administración de alguna caja o de kutxabank que no sé por qué no pide de kutxabank

que dejaron de existir como usted sabe hace tiempo no gestionan ni como banco ni el negocio bancario hace tiempo es kutxabank no sé por qué nos pide pero a mí lo que más me sorprende es que usted nos diga

y digo me sorprende porque debe ser el único ciudadano en españa que no se ha enterado que ya el banco de españa

que nos venga usted a decir aquí que son las diputaciones y el gobierno vasco los que tienen que hacer una investigación no sé si también usted ha dejado de ser europeísta y tampoco cree

por eso le digo que pues bueno como ya he visto exactamente a qué ha venido usted aquí que es a ponerse medallas ajenas

porque si le votamos en contra es que estamos en contra de que se investigue no sé qué y como votar a favor de lo que usted plantea es imposible porque usted nos dice insta las diputaciones forales y al gobierno vasco dentro de sus competencias a que haga pues ya le digo yo sus competencias son cero por lo tanto

el punto que hoy se nos propone creemos que debería ser asumido por todos los grupos aquí presentes como un mecanismo de control sobre el ente financiero más importante que tuvo este país

para poder dotarnos de los mecanismos suficientes para poder afrontar con ciertas garantías las consecuencias de la economía que nos impone el capital a las instituciones públicas y a la ciudadanía

sobre todo si asumimos por lo menos nosotros y nosotras así lo hacemos

y banco central europeo no solo fueron un absoluto fraude sino que sirvió además para que los grandes bancos y cajas se hiciesen con el control total del mercado financiero privado y que tras la destrucción de la soberanía financiera pública

las políticas económicas sociales y laborales estatales a través de la presión que realizan sobre las instituciones públicas a través de la deuda arazoa da

usted no achaca ningún tipo de responsabilidad sobre la actual crisis a la mafia financiera liderada por botín

mario fernández entre otros considera que estas son personas que no han abusado de su poder para enriquecerse a costa del trabajo de los y las trabajadoras usted no asume que a nivel internacional quienes obligaron a modificar las leyes reguladoras

usted no sabe que todos esos productos financieros que nos trajeron a la crisis fueron creados por esos profesionales que usted propone que dirijan nuestros designios

berdin berdin helduko ginateke y la razón es simple necesitamos controlar el sistema financiero para que deje de ser una herramienta al servicio de los más poderosos y estar

aquellas personas que fueron elegidas para realizar el control público en los consejos de las cajas acabaron mimetizándose con lo que viene siendo un consejo de un banco privado al uso

que no era otra que la de velar por el bien común ese que debía ser su único objetivo el de velar por el buen uso de las cajas y evitar excesos no lo cumplieron eso es lo que debemos criticar y poner medidas al respecto pero no hacer desaparecer todo el control público sobre las entidades financieras como quiere el señor maneiro

horiek guztiak herritarrok jakin beharko genuke horiek eta askoz gehiago voy a centrar el debate en relación a kutxabank para defender la necesidad no solo de una herramienta financiera pública sino también su necesidad de transparencia porque van ambas unidas por un lado hay que recordar porque parece que se nos olvida ya que el gobierno vasco al igual que otras de nuestras instituciones mantenían y mantienen una relación preferente con kutxabank

así mejor o peor aceptábamos y utilizábamos esta herramienta financiera cuyos activos venían del ahorro de la clase trabajadora para el bien común y el desarrollo social

unos beneficios a través delos intereses financieros dicho beneficio se debería utilizar tanto para mantener las estructuras de las cajas como para realizar la obra social hablando claro la sociedad salía beneficiada en dos ocasiones la primera a la hora de invertir en lo público los ahorros de los y las trabajadoras y por otro lado a través de los beneficios que eso generaba a la hora de cómo se revertían

porno hablar de condiciones ventajosas a la hora de acceder a los prestamos etcétera pues bien con el proceso de privatización y banquerización actual que nos llevará

pasaremos a que la relación preferente que podían tener las cajas a la hora de financiar las instituciones

desaparecerá porque seamos sinceros el beneficio hoy se encuentra en la especulación financiera

son depredadores y acumuladores de capital así kutxabank pasará a imponer nuevos criterios en las futuras relaciones financieras con nuestras instituciones

no volverán a ser ya más para la obra social porque volvamos a ponernos serios en esto invierte en un banco o empresa es para conseguir rentabilidad económica que querrá capitalizar y no que esa rentabilidad

así perdemos esa doble función así nos arrastramos hacia una sociedad mucho menos cohesionada a nivel social ahora vamos a analizar otra consecuencia de la privatización de kutxabank

y las extintas cajas vascas ahora son activos puramente privados que serán rentabilizados por los inversores privados y nunca por la sociedad vasca es algo similar a lo que pasó con iberdrola y otras empresas públicas que consiguieron contratos públicos casi a perpetuidad

casualidad por supuesto otra casualidad es que los beneficios multimillónarios que les han dado esos contratos con cláusulas abusivas

y a los bolsillos de los que ayudaron en su privatización eso va a volver a pasar con kutxabank vamos a regalar todos sus activos construidos por el esfuerzo ahorrador de la clase trabajadora

por todo ello y volviendo al tema creemos que aquellos que nos han llevado a la privatización y este modelo de bancarización y que la han gestionado deben de ser auditados y las cuentas también y debemos hacerlo ya

algunos dicen que lo único que se hace es poner en duda dicha gestión nosotros y nosotras décimos que la única manera de poder confiar sin tener que hacer un acto de fe es mediante la auditoria cuando hablamos de trasparencia en lo público también hablamos de auditar la gestión de los responsables políticos

debemos aclarar también si ha habido bufetes de abogados que han cobrado sueldos millónarios al amparo de este proceso

ayudas técnicas para la privatización debemos auditar donde han ido esos cientos de millónes de la obra social que han desaparecido de dicha obra social ya que en el proceso de intercambio entre el proceso de fundaciones de pasar de ser fundaciones a fundaciones bancarias por haber sido provisionadas

y recuperar con ello el concepto que tenían las cajas y esa doble reversión social de la que he hablado poniendo a kutxabank al servicio de la ciudadanía y no de los especuladores

que no se quiere aceptar la auditoria por varios uno porque algunos partidos de los que están aquí se les ha perdonado condonado o renegociado millónes de euros que debían a las entidades financieras de kutxabank por prestamos

por eso euskal herria bildu tiene un principio claro de funcionamiento no debemos nada a nadie

a la clase trabajadora o con aquellos que echan a nuestros vecinos y vecinas de sus casas ni con aquellos que mientras hablan de la necesidad de seguir avanzando en el empobrecimiento de los y las trabajadoras ganan sueldos millónarios pero cómo vamos a conseguir esto si aquellos que han privatizado kutxabank

a sus amigos y estos son el partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi y partido popular qué transparencia podemos esperar

de los que no la han tenido en todo el proceso de fusión bancarización y privatización ninguna

banku zentralagatik me dirán que qué le hace pensar que en las cajas vascas haya podido pasar algo similar

y si usted se hubiera tomado la molestia en un ejercicio de honestidad en un ejercicio de rigor en un

a un parlamentario señor maneiro usted sabría quienes eran como usted dice los miembros del consejo de administración y de la asamblea general usted sabría cuántas veces se han reunido los distintos órganos usted sabría

cuántas personas han asistido a cada una de esas reuniones

sabría también cuáles son los mecanismos establecidos por la caja para preservar la independencia del auditor externo de los analistas financieros y de los bancos de inversión

y ustedes sabrían cuántos ejercicios han sido auditados por estas auditorías

que ha sido en concreto en el caso de la bbk que es la que tengo yo el veinticuatro coma veinticuatro por ciento es decir durante ocho ejercicios llevan más de treinta años treinta y tantos años auditándose continuamente las cuentas y toda esta información está disponible para usted para usted y para todos nosotros eta herritar guztientzat

si hubiera seguido trabajando con rigor y documentarse bien también hubiera visto que en la página web al alcance de todas las personas también tenemos este documento en cualquiera de las tres webs puede usted entrar en bbk puede usted entrar en vital puede usted entrar en kutxa le digo dónde está

y encuentra todos estos documentos hubiera encontrado informe anual sobre remuneraciones de los miembros del consejo de administración y comisionados de la comisión de control

y hubiera conocido la política de remuneraciones de las cajas y hubiera sabido que exclusivamente la percepción de dietas por asistencia y desplazamiento

cuánto también ciento noventa y cinco euros netos después de habérseles practicado la correspondiente retención tributaria

indemnizaciones pactadas o pagadas a miembros del consejo de administración no aplica hubiera usted sabido también remuneraciones en especie no se aplican otros conceptos retributivos no se aplican usted hubiera sabido todo esto

y no con lo que es práctica y estrategia habitual de upyd y usted

suya también ustedes meten todo en la misma bolsa de ropa sucia con un objeto que todo salga sucio o por lo menos con hedor ustedes quieren esparcir el hedor que pringue a todos y ustedes aquí representantes del bien hay que ser serios

toda esta información está al alcance de todas las personas

a los gestores de las tres cajas que han permitido que mientras un sistema financiero entero ha caído un sistema de cajas haya caído aquí

la entidad financiera más solvente del sistema financiero español y una de las más fiables de la eurozona esa es la realidad y a qué les condena a usted señor maneiro a la presunción de culpabilidad supongo que todo por euskadi

la marca cajas vascas kutxabank zure ekimenaren kontra bozkatuko dugu

sí gracias presidenta señora gorospe tengo la cabeza en euskadi tanto es así que queremos saber si los mismos que nos han robado allí

han actuado del mismo modo que han actuado en otras partes de españa porque de esas otras cajas de ahorros también se nos decía que funcionaban perfectamente mientras que posteriormente se hundieron nadie conocía el hecho cierto demostrado ahora en caja madrid de que existían tarjetas opacas únicamente se ha podido saber gracias a la querella planteada por upyd sí señor damborenea se ha sabido de la existencia

en caja madrid gracias a las denuncias de upyd y se han conocido muchos hechos delictivos en otras cajas de ahorros gracias a las querellas de upyd esta es realidad hay muchos datos que dan al menos qué pensar y desde luego nos aconsejan que pidamos

investigación para saber si aquí también se utilizaron tarjetas opacas que supongo que en esos documentos que usted nos ha leído pues evidentemente no aparecen

era una práctica conocida y legal en las corporaciones del mundo entero y que sigue habiendo esas tarjetas en las distintas cajas de ahorro y decía que

perfectamente varios de los consejeros de caja madrid han denunciado el presunto uso generalizado de las tarjetas de crédito no declaradas en fin hay mucha información sobre la materia y además sabemos que caja madrid como la mayor caja en el estado era el ejemplo seguido por el resto de entidades

de modo semejante tenemos también las declaraciones realizadas por parte del gobierno que anuncian la apertura de determinadas investigaciones a grandes empresas y la posibilidad de que se investiguen también la totalidad de las cajas de ahorros

ha señalado la posibilidad de que hayan empleado tarjetas opacas en otras antiguas cajas de ahorro por lo tanto sospechas hay y sospechas hay

señor prieto ni desprestigiar a nadie señora gorospe lo cierto es que la alarma y la sospecha están ya perfectamente extendidas entre la ciudadanía nosotros lo que no queremos que haya es impunidad y delictivos y delitos claros se han cometido en otras cajas de ahorros que estaban gobernadas por los mismos que han gobernado las cajas de ahorros vascas por los políticos por sus políticos por sus partidos políticos que es los que han llevado a cabo este desfalco

del dinero público la última vez que señor prieto usted dijo que upyd hacía

del tribunal vasco de cuentas públicas resulta que ahora el partido socialista incluye entre sus medidas de lucha contra la corrupción la profesionalización

más pronto que tarde tanto el partido popular como el partido socialista vengan a presentarlas en rueda de prensa la última vez que usted me acusó de hacer antipolítica fue cuando defendí

la semana pasada su líder defendió la profesionalización del tribunal de cuentas públicas de todos los tribunales de cuentas públicas las cajas de ahorros han estado bien gestionadas insisten ustedes

muy mal gestionadas y muchas cajas de ahorros han actuado de forma semejante

porque estaban dirigidas por las mismas personas por los mismos partidos políticos por lo tanto

que hay razones suficientes para que se pueda abrir sin presuponer nada una investigación que se aclare

la fiscalidad se analice la posible utilización de estas tarjetas

etcétera me hablan ustedes de órganos de control pero lo cierto es que los órganos de control

ni la comisión nacional del mercado de valores ni el banco de españa ni ningún otro porque están también politizados por lo tanto únicamente a través

se investiguen y efectivamente nosotros hoy mismo vamos a poner en manos de la fiscalía toda la información de la que disponemos para que cuanto antes la fiscalía superior

investigue la gestión llevada a cabo por las cajas de ahorro vascas del mismo modo que hemos planteado otras cuarenta denuncias semejantes en los últimos días para que se investiguen el funcionamiento la gestión las remuneraciones la tributación o la existencia

en cada una de las cajas de ahorros que han existido en los últimos tiempos en españa y que ustedes han saqueado durante largos años ustedes han llevado al país a la ruina nosotros no queremos en fin

queremos cuestionarlo todo lo que nosotros queremos es que no haya ningún tipo de impunidad

no vengan ustedes a hacer ruedas de prensa con lágrimas de cocodrilo con

a la ciudadanía no hace falta que ustedes pidan más perdón a la ciudadanía lo que queremos es que se haga justicia y que no haya ningún tipo de impunidad sí

vamos a llevar hoy mismo este asunto a la fiscalía para que

evidentemente porque estaban dentro ustedes estaban dentro
y por eso no quieren que se investigue eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

en más de una ocasión de hacer la antipolítica y le vuelvo a reiterar que hace la antipolítica y la acaba de hacer otra vez una vez más y lo va a seguir haciendo porque probablemente esa es

usted tiene presente mire acaba de decir ahora mismo aquí en esta réplica que usted no presupone nada a nadie pero acusa a todo el mundo usted no presupone nada pero acusa a todo el mundo esa es la antipolítica

no tener un solo elemento de prueba y venir aquí a una cámara política al parlamento vasco a tratar de ensuciar la vida pública de esta comunidad

y a las personas a su buen hacer y a las responsabilidades que han ejercido públicamente y transparentemente en esta sociedad oiga

vaya pero por qué pierde el tiempo por qué colabora con los que parece que están manchados

por qué hace perder el tiempo por qué por qué usted da opción incluso a que se puedan perder pruebas o se puedan perder indicios que demuestren un delito por qué

aquellos elementos probatorios para perseguir conductas que sean

a la inspección de hacienda por qué no ha denunciado a ningún miembro de ninguna caja

no ha tributado por aquello que ha recibido a lo largo de su gestión por qué no lo ha hecho si usted tiene eso vaya y hágalo y no manche y no trate de ensuciarle todo mire en nombre del partido socialista desde la responsabilidad del partido socialista no ha habido nadie que haya metido la mano en la caja

personalmente ha sido bajo su responsabilidad y contra el partido socialista y contra los que defendemos y los que estamos en el partido socialista con los que nos vemos salpicados de esa actitud absolutamente deshonesta y a veces delictiva yo denuncio todos los actos de corrupción porque los pago más que usted porque los pago porque hay personas que han hecho actos delictivos perteneciendo a mi partido y porque luego hay

que viene aquí a meter todo en el mismo saco y esto es la antipolítica y esto es sucio y esto no es democrático y esto es

calidad democrática y es de mucha bajeza lo que usted hace permanentemente

acusando a todos de actos delictivos que han cometido algunos

el nombre del partido socialista o la confianza o la representación que les ha dado el partido socialista para lucrarse personalmente

sobre esas personas pero usted no me va a acusar a mí de esas responsabilidades y no le va a acusar a mi grupo de esas responsabilidades porque sería tanto como acusarnos de colaboración con esos actos delictivos y yo eso no se lo voy a consentir y no se lo voy a tolerar porque es falso pero además es antipolítica

absolutamente despreciable su actitud es absolutamente despreciable yo defiendo la honorabilidad el respeto el buen hacer la entrega

la inmensa mayoría de los socialistas que han peleado contra todo han peleado contra la dictadura han peleado en defensa del constitucionalismo en la guerra civil han peleado contra la injusticia

hemos peleado contra el terrorismo todos nosotros hemos hecho eso

generaciones tras generaciones y usted no va a venir aquí a difamarlas a insultarlas

hoy existen oportunistas como usted porque ha habido personas

señor maneiro le voy a leer lo que viene en un periódico para más que nada

que se hace estas preguntas para que la gente diez claves sobre las tarjetas opacas primera pregunta cómo ha salido a la luz el escándalo y empieza diciendo josé ignacio goirigolzarri empieza así pero luego nos vamos a la

entonces le voy a leer la respuesta que se da y no me crea a mí crea

eliminó la retribución a través de esas tarjetas en cuanto tuvo conocimiento de ella y entregó la auditoría es decir se auditan las cosas digo por si alguien no se entera de que hay auditorías al fondo de reestructuración ordenada bancaria frob no sé si sabe usted de quien

creo que rosa díez ni usted están ahí creo

que es el máximo accionista de bankia una vez que el frob recibió el informe de auditoría se lo envió a la fiscalía anticorrupción oiga esto está en la prensa no ha sido upyd

ni con sus denuncias pero le voy a decir más le puedo decir más la semana pasada

andan lentos o han metido ustedes una denuncia para ponerse ha planteado otra denuncia por doscientos diez millónes por nova caixa galicia si usted le hubiera seguido sí sí

que creo que no es de upyd todavía todavía no es de upyd en el congreso de los diputados que explicó que llevan ya denunciados más de

en cajas intervenidas es decir yo no sé si a usted lo que le molesta es que el sistema funcione

pero qué quiere que le diga ha sido el frob y el gobierno el que lo ha denunciado a la fiscalía y a los tribunales

no ha sido usted con las auditorías que se hacen

hacer la política que cada vez que leen algo en el periódico voy corriendo a poner una denuncia a ver si luego digo es gracias a mí que aquí se ha descubierto algo pues gracias a ustedes todavía no hemos descubierto nada

ninguno otros tienen problemas con el tribunal de cuentas a la hora de explicar sus cuentas

quiero recordárselo quiero recordárselo porque claro aquí hay lo que hay y cada uno tiene lo que tiene

sí le voy a decir lo más lamentable de toda su actuación le voy a decir lo más lamentable de toda su actuación que es que nos ha repetido dos veces lo mismo

que es la frase más lamentable y por la cual usted se descalifica hoy aquí usted solo usted solo qué quería hablar de las tarjetas de bankia pues hablamos de las tarjetas de bankia

usted no lo sabe usted no lo sabe no no me diga sí no me diga sí no me diga sí

lo que ha hecho usted porque yo le he dicho en mi primera intervención que con su propuesta usted no quería investigar nada porque le manda investigar a quien no tiene competencias para investigar

tiene datos y es incapaz de darnos aquí un solo dato un solo dato díganos un dato de alguien de alguien no no has dicho nada ha venido usted a hacer aquí el paripé a usted

la vida pública ir a por los corruptos meterlos en la cárcel le importa un comino porque además si tuviera tantas pruebas

al juzgado sabe porque no va al juzgado porque luego se le puede volver en contra por estas cositas es que existe también el delito el de acusación falsa

y va a la fiscalía deja el pastel y yo ya he hecho usted sabrá lo que

los de bildu a ver si alguien le explica al representante de bildu que la obra social en el beneficio que si no hay beneficio no hay obra social no sé si alguno en todo el grupo es capaz de explicárselo al representante

kutxabank se mantenga como una entidad pública es euskal herria bildu y

no solo de esa privatización sino de la bancarización y de todo lo que se ha hecho con anterioridad lo cual también quiere decir bastante

o creer que seguramente ustedes tienen bastante que esconder pero es que cuando usted nos dice

si analizamos los test de estrés bancario

o cómo se han realizado esos test de estrés bancario se han realizado y por eso tiene kutxabank tan buenas notas se ha hecho

y como seguramente nos podría enseñar a todos el señor damborenea lo que se provisionan en este caso han sido los beneficios para uno no tener

todos los prestamos que podían ser de dudoso cobro lo provisionas en base a beneficios y esos beneficios casualidad que era algo que se había comprometido kutxabank para hacer con la obra social

eso yo creo que lo tengo claro usted lo tiene claro pues sigamos una vez que entren lo que puedan ser los inversores a través de la bolsa me imagino que esos inversores muy filántropos no serán me imagino que querrán rentabilizar su capital es decir querrán recuperar la inversión que han realizado

van a aceptar que exista obra social de aquí a dos años evidentemente no

o no o que es bueno que kutxabank tenga beneficios porque más allá de la defensa a ultranza que ha realizado la señor gorospe que solo la faltaba la camiseta de kutxabank que ahora que es privada

nos genera dudas y nos genera dudas porque lo que no defienden de un control público que es lo que estamos defendiendo nosotros cosa que no realiza el señor maneiro

y la eliminación del control público sobre el sector financiero ustedes lo que hacen es ponernos datos tales como fíjense si ha sido auditada que ha sido deloitte que le ha auditado de manera externa

por hacer si hacemos todos la labor parlamentaria para no poner ejemplos que nos puedan venir en contra fue quien realizó el balance a bankia dos mil once también

fue el que auditó a todas las cajas que han sido nacionalizadas si hacemos bien el trabajo parlamentario

le atribuyó infracciones muy muy muy graves en todas sus auditorías

no es ejemplo de absolutamente nada

también auditaba a todos aquellos bancos que fueron nacionalizados en el exterior todos aquellos pufos financieros que nos han traído aquí estaban entre otros auditados por deloitte entre otros

lo que hace es cobrar y lo que el informe que realiza es en base a lo que quiere que se les diga

en todas las auditorias que han realizado usted nos está hablando también de que el señor maneiro y yo vamos de la mano

me imagino cinco cinco son las causas abiertas en epsilon hiriko

y así en todas es que el problema es otro el problema es que ustedes quieren esconder eso y lo único que hemos pedido aquí nosotros para defender que kutxabank pudiese seguir siendo y tuviese

en la defensa de los derechos de la ciudadanía y sobre todo para poder ser utilizado por los entes públicos para defender en estas circunstancia de crisis a la ciudadanía los únicos

el carácter público y debería estar controlado público y quizás debería estar

nombraron en su momento para ir de representantes allí es que defendiesen lo único que tenían que defender que eran

de la ciudadanía al ponerles ahí que les defendiesen a la hora no de especular y de buscar mayores beneficios con dichas especulaciones sino que su dinero el de sus ahorros fuese utilizado de manera honrada y no para comprar bonos basura

es lo que deberíamos estar exigiendo aquí y mientras tanto lo que hemos hecho es privatizarlo ponerlo en manos del capital privado

y sabe usted algo más los únicos que van a rentabilizar todo el esfuerzo de esos ahorros de los trabajadores van a ser los nuevos inversores de kutxabank

participado en esa estafa eskerrik asko lópez de munain jauna

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea fíjese si van de la mano en todo que hasta en eso de somos los únicos que defendemos coinciden

misma la misma estrategia en mil casos es que son clones clones en estrategia clones pringar

a todos ustedes los únicos en defender ustedes los únicos en defender todos juntos yo señor

la verdad es que o en su primera intervención

el objeto del debate la verdad dudaba digo este se ha confundido de debate pero es que al oírle la segunda intervención digo se ha confundido segundo o no o es que ustedes tienen

que sirve para todo el mismo discurso que sirve para todo o se ha confundido de debate o es que ustedes tienen un discurso el mismo sea cual sea el objeto de debate

son un grupo grande que se fueran ya centrando en cual es el objeto del debate maneiro

expuesta en la página web hay mucha información decirles que eran ciento noventa y cinco euros netos los que cobraban y además

de seis sesiones por año incluso se establecía el máximo de sesiones queremos saber si los mismos que nos robaron allí nos han robado

kokatu zaitez euskadin porque es que los de allí no son los mismos que han estado aquí no son los mismos y usted está no se

cuerpo presente y mente ausente o cuál es su estado pero es que desde luego está usted aquí pensando allí y claro eso da como consecuencia lo que da

sí claro pero no las vascas porque mientras las cajas mal gestionadas han caído aquí las tres cajas de la comunidad autónoma

sin necesidad de inyección de dinero público alguno han creado la entidad financiera más solvente le vuelvo a decir del sistema financiera español y una de las de más credibilidad

esa es la diferencia claro que ha habido cajas mal gestionadas pero no las de aquí y usted vuelve a hacer lo mismo mezclar y a repartir

exactamente va a ir a la fiscalía dice ahora y qué le va a pedir

hay alguna prueba contrastada tiene usted algún indicio señor maneiro y claro no nos ha dicho nada

si tuviera uno usted lo hubiera dicho usted va a llegar a la fiscalía con la caja me imagino que con caja y le va a decir qué oiga señor fiscal

investigación preventiva por si acaso mire

mire cuánto tiempo cinco años diez años veinte años treinta años cuarenta años cuánto qué le va a contar investigación preventiva qué va a hacer

la presunción de culpabilidad eso es lo que va a hacer eskerrik asko eskerrik asko gorospe

yo creo que ya superado en relación con los modelos lingüísticos y lo trae a colación de un acuerdo que el veintinueve de septiembre suscribieron gobierno vasco y gobierno central en relación con una revisión del recurso planteado por el gobierno vasco a la lomce en relación con ese acuerdo

de su propuesta sobre dos premisas una a nuestro entender falsa porque parte de la interpretación equivocada por no decirtorticera

con ese acuerdo cuando se dice efectivamente que el euskera pasa a ser una lengua de segundo nivel y

responde a la realidad en relación con la defensa y el refrendo que se hace al sistema vasco de modelos lingüísticos efectivamente como un sistema que tiene y que debe garantizar la libertad de las personas la libertad de las familias en euskadi

tanto el euskera como el castellano como lengua vehicular de la enseñanza bien y además a partir de esas premisas usted hace una serie de planteamientos y una serie de propuestas que nosotros entendemos

si las votásemos a favor no supondrían más que un brindis al sol no suponen nada no aportan nada es decir reconocer el euskera como idioma escolar del sistema educativo lo es al ser lengua oficial de araba

ya lo es señor isasi y usted lo sabe reconocer el estatus del euskera en álava bizkaia y gipuzkoa que es el que le corresponde a la lengua oficial claro

es lengua cooficial usted repite siempre que es lengua

pero efectivamente nadie ha puesto en cuestión ninguna de las propuestas que usted hace en su moción

cada uno de los cinco puntos en relación con la competencia lingüística asumir la responsabilidad de como fija la ley

la etapa obligatoria efectivamente con un nivel práctico

que como hemos dicho en muchas ocasiones la euskaldunización no es el único de los objetivos de nuestro sistema educativo el sistema educativo múltiples objetivos uno primero que es la formación integral de la persona la formación integral de la persona y efectivamente una formación de calidad

conseguir esos niveles de capacitación lingüística en ambas lenguas pero efectivamente no es el único objetivo ni el prioritario de nuestro sistema educativo la escuela vasca no está al servicio exclusivo de la euskaldunización ni puede ni debe estarlo efectivamente no lo puede estar

en todo caso se plantea usted refuerzos que se vienen ya practicando desde hace ya muchos años en nuestro sistema de modelos

el modelo a es un modelo reforzado en la carga horaria del euskera cosa que nos gustaría saber efectivamente si en el modelo quinientos se ha querido

teniendo en cuenta las realidades sociolingüísticas del entorno en cada uno de los territorios aquí como usted sabe señor isasi no se ha respetado desde el primer momento la ley de modelos lingüísticos prácticamente se ha traicionado su espíritu a través de sucesivas modificaciones del mapa escolar puesto efectivamente en riesgo la calidad en muchos centros educativos se ha desplazado al profesorado se ha condicionado la elección y la voluntad de las familias en aras a forzar los ritmos y a imponer el modelo quinientos como el modelo principal y mayoritario de la escuela nosotros siempre hemos defendido que hay dos maneras de llevar adelante las políticas lingüísticas hay quien ha apostado como ustedes siempre en política lingüística por la imposición por forzar los ritmos hay quien ha apostado como ustedes siempre por condicionar la voluntad de esta sociedad la voluntad de las familias que se han negado siempre a respetar

la lengua vehicular de la enseñanza que se niegan a reconocer la necesidad pedagógica de garantizar también la presencia de la lengua materna en la enseñanza en la educación de nuestros hijos y

que la lengua materna de la inmensa mayoría de los vascos y vascas es el castellano la lengua materna de la mayoría de esta sociedad es el castellano nosotros desde luego los vascos del partido popular

por el respeto de los derechos lingüísticos de todos y hemos traído aquí muchas denuncias en muchas ocasiones no se han querido respetar los derechos lingüísticos de todos creo siempre ha habido quien ha pretendido también con la excusa de la defensa de determinados derechos lingüísticos

vulnerar derechos fundamentales nosotros hemos querido siempre apostar por la promoción por la promoción del euskera por el consenso en las políticas lingüísticas creemos

instrumentos al servicio de las personas al servicio de la convivencia instrumentos al servicio de las personas y son las personas somos los ciudadanos y las ciudadanas los sujetos de los derechos y no las lenguas las lenguas tienen que ser un instrumento una herramienta al servicio de las personas no al contrario

quienes tenemos que poner todos nuestros derechos al servicio de determinados objetivos lingüísticos de quienes pretenden imponer un determinado ritmo en este caso en la euskaldunización de nuestro sistema educativo esta sociedad ha hecho un esfuerzo enorme

en los tres territorios han hecho un esfuerzo enorme especialmente en los entornos sociolingüísticos donde el euskera prácticamente apenas tenía presencia quienes más esfuerzo han hecho en esta sociedad han sido los pueblos las ciudades los territorios donde

era el castellano la lengua vehicular la lengua de uso social la lengua materna

más esfuerzos y donde esta sociedad ha hecho más esfuerzo pero nunca

no se ha querido reconocer ese esfuerzo se ha tratado de permanentemente forzar los ritmos forzar los ritmos muchas veces con el ánimo de instrumentalizar

ocultando otros intereses otros intereses que vulneraban incluso derechos fundamentales como el derecho al trabajo el derecho al trabajo de muchos profesores que se veían apartados de la docencia

llegaban otros llegaban profesores euskaldunes cuando efectivamente se veía mermado y cercenada la posibilidad de que todos aquellos

viesen negadas las propias oportunidades al acceso a esa docencia nosotros hemos querido siempre apostar

a educar a sus hijos en cualquiera de las dos lenguas cooficiales efectivamente ustedes están

pero no pueden mantener no pueden seguir manteniendo después de que el gobierno vasco ha firmado ese acuerdo con el gobierno central no pueden seguir manteniendo que efectivamente el euskera se ha quedado apartado como lengua de segunda efectivamente usted sabe perfectamente que el euskera tiene un tratamiento específico exactamente para que todas

del euskera dependan en exclusiva de la comunidad autónoma del país vasco en todo caso es verdad que la lomce y nosotros lo defendemos así refrenda un sistema de modelos que garantice

cualquiera de las dos lenguas puedan ser elegidas como lengua vehicular de la enseñanza nosotros hemos llegado a un acuerdo

y con el grupo nacionalistas vascos un acuerdo de transacción que vuelve a reivindicar lo que esta cámara ya ha aprobado en otras ocasiones vuelve a reivindicar efectivamente que se ponga los medios que se busquen los acuerdos y los consensos necesarios pero que se apueste

sosteniéndose sobre el actual sistema de modelos que se apueste

un camino hacia el trilingüismo hacia una apuesta clara por el inglés incluso por una cuarta lengua en función de los proyectos educativos de los intereses de las familias y de la libertad de elección

garantizar a todas las familias en el país vasco que tanto el euskera como el castellano puedan seguir siendo lenguas vehiculares de la enseñanza y ninguna de las dos lenguas oficiales ninguna de nuestras dos lenguas propias el euskera y el castellano

señor isasi he atendido a su razonamiento me ha parecido que usted ha hecho un esfuerzo honesto y que ha traído una propuesta fundamentada en el recorrido legislativo del que nos hemos dotado trae usted un debate por tanto

sobre el papel sobre su proposición no de ley todos hemos entendido superado

hemos visto que usted lo que venía a aproximar era una superación de los modelos lingüísticos

afirma que los modelos lingüísticos están superados

y he atendido con mucho ánimo el desafío que usted ponía para el siglo veintiuno estableciéndolo precisamente en las lenguas

ahí se ha parado usted por lo tanto todo lo que traía en su paquete era la superación de los modelos lingüísticos

usted quiere superar los modelos lingüísticos para convertirlos todos

extraordinariamente estancos para la educación vasca y se precisa modelos mucho más flexibles en la realidad he de decirle

de combinación de las dos lenguas oficiales con atención preferente al euskera el sistema está todo él hablando y escribiendo y utilizando el euskera como vehículo para trasmitir el conocimiento en la mayoría de él no hay más que ver que las entradas al sistema

modelo a reforzado ya con euskera desde hace ya algún tiempo pero usted quiere le insisto con la pregunta

superar los modelos lingüísticos para convertir todo en un modelo quinientos o quiere superar los modelos lingüísticos para que efectivamente sean unos modelos flexibles territorios flexibles que incorporen el euskera

el castellano porque también tiene que ser formalizado en el ámbito escolar único lugar organizado para hacerlo y una lengua extranjera

probablemente el inglés en la mayoría de los casos porque el inglés se ha convertido

por tanto es para eso es decir podremos pensar

en modelos trilingües que efectivamente pongan el máximo acento en la lengua oficial en diglosia como es el euskera sin preterir el castellano y trabajar una lengua extranjera

para el siglo veintiuno en la europa dos mil veinte su modelo porque si es ese su modelo seriamente podríamos establecer formatos para trabajar sobre ese modelo

lo que no parece terreno adecuado es pretender un cambio de modelos para convertirlo todo en un modelo estanco porque ahí señor mío ahí estamos vulnerando libertad de elección

respeto a la sociedad y es decir a las comunidades sociolingüísticas diferentes etcétera y hemos de decir que lejos de usted señor isasi tener frustración por el camino recorrido debería deberíamos todos compartir

pero sí un buen reconocimiento al esfuerzo realizado por los profesionales de la educación que he de recordarle señor isasi que para algunas personas han sido más fácil que para otras como le decía el señor oyarzabal

solo un cinco por ciento de las plantillas de profesorado era bilingüe fíjense ustedes un cinco por ciento mientras que hoy en la actualidad la totalidad de las plantillas fíjense ustedes el camino que hemos recorrido cuando hablamos de recuperación del euskera yo creo que no deberíamos hablar de recuperación del euskera sino de

es decir de implantación del euskera porque cuándo en la historia el euskera ha tenido tantos hablantes cuándo el euskera ha tenido tantas personas conocedoras en número y en calidad del euskera por tanto yo creo que

cualquier comparativa con cualquier país que esté en un trabajo de recuperación de su patrimonio cultural

no puede ser más favorable a la comunidad vasca

pero es que además este parlamento cada vez que ha sido preguntado sobre su voluntad democrática en relación al euskera siempre ha respondido lo mismo siempre ha mantenido una actitud favorable al fomento del euskera desfavorable

y favorable también al no mantenimiento de ninguna situación de neutralidad

por tanto yo creo que ese reconocimiento debe hacerse a los profesionales de la educación porque ha sido la escuela la que fundamentalmente

el motor de este cambio a las familias porque las familias también han hecho una apuesta por el sistema bilingüe

nos conviene deberíamos hacernos otras preguntas mucho más contemporáneas es decir

en este mundo globalizado sin perder nuestra personalidad porque esa no la debemos ni podemos perder cómo podemos avanzar para hacer que nuestros alumnos y nuestras alumnas no estén en desventaja en situación de desigualdad cuando tienen que competir

de mundo globalizado cómo podemos impulsar la movilidad cómo

de qué manera hacerlo por eso hablamos en la enmienda que lo hemos hecho que por lo

tratar de trasladar de otra manera en esa enmienda queremos que usted también entre en ese debate es decir que hagamos una cosa

para ver si podemos abrir los campos y llegar realmente a un acuerdo entre todos pero un acuerdo que sea razonable tanto

como para los euskaldunes tanto para aquellas zonas sociolingüísticas que no tienen el euskera como para una comunidad en la que ciertamente casi el ochenta por ciento de las personas nacen con el castellano como lengua materna y que tiene que hacer el esfuerzo

tres pero tenemos una gran ventaja en la escuela y es que los filólogos sabemos y todo el mundo ya sabe que hay una transferencia de conocimiento entre

se traslada a la otra y a la otra yo le invito a que entre por fin

porque usted sabe que con el marco de educación trilingüe hemos tratado de investigar científicamente y lo hemos logrado y lo ha hecho la universidad de cambrils y pisa y lo hemos logrado investigar como digo

utilizando una lengua extranjera se pierde conocimiento o se pierde en euskera y resulta que no se pierde y sino se pierde y se avanza en la lengua extranjera

al euskera por qué no hacerlo si este es el desafío de la sociedad contemporánea por tanto

vamos a ver si podemos llegar a lugares de encuentro esto es lo importante llegar a lugares de encuentro con su debate y con el nuestro pero ciertamente

el siglo veintiuno es el siglo de las lenguas yo creo que una aproximación

ekimen hau ekarri digu hemos debatido en muchas ocasiones sobre esta cuestión en este parlamento desde un punto de vista u otro pero el debate siempre termina en lo mismo es más de lo mismo la enmienda que nuestro grupo ha presentado

al tratamiento de las lenguas en el sistema educativo vasco por un lado instamos al departamento a promover la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe

preferente necesario y por qué hablamos de un tratamiento preferente pues es obvio para compensar la desigualdad de uso social entre las dos lenguas oficiales el objetivo de todo ello

una competencia comunicativa práctica y eficaz en euskera y castellano y suficiente en la primera lengua extranjera eta isasi jaunak

pozten gara eso en ningún caso excluye la posibilidad de adquirir conocimientos básicos en una segunda lengua extranjera siempre que los centros lo tuvieran previsto en su proyecto lingüístico

señor isasi naturalmente yo he defendido el conocimiento del euskara para todos los alumnos y alumnas

a lo mejor me tomo el trabajo de demostrárselo objetivamente con documentación siempre he creído

es decir ya ha pasado mucho tiempo desde que se pensaba que el bilingüismo estropeaba las cabezas ha pasado mucho tiempo y que tres lenguas incluso mejoran la capacidad del aprendizaje la agilidad en los conceptos etéctera pero como decía se acuerda usted de joshua fishman fishman un judio del bronx quería recuperar lengua también y decía schools

decía las escuelas en sí mismas solas por sí mismas no son suficientes para revitalizar las lenguas es necesario que la sociedad también asuma y esa es la cuestión es decir aquí el esfuerzo capital importante importantísimo

y lo ha hecho la escuela casi le voy a decir en solitario en solitario muy en solitario por tanto

para observar todo el camino que hemos hecho y es verdad

pero eso está superado qué no está superado claro si efectivamente la transferencia de conocimientos se pretende hacer como vasos comunicantes entre la cincuenta uno la cincuenta dos la cincuenta tres e incluso la cincuenta cuatro

están siendo utilizadas vehicularmente en un tiempo del horario escolar que sirva como umbral pues entonces claro

y también se produce otras cosas se producen otros fenómenos como el de que se transfiera el conocimiento pero la expresión falta por tanto hay que trabajar con

en un momento en un tiempo del horario escolar que sirva como umbral suficiente para que se produzca ese efecto

también yo quiero que usted entre en eso y que vea que el marco de educación trilingüe

al euskera que no se pierde euskera porque se utilice un mínimo de un veinte por ciento

para una lengua extranjera y que al contrario los niños y niñas de la enseñanza secundaria obligaria llegan al bmenos uno

en un sesenta por ciento oiga frente al grupo de contraste

por tanto yo quiero que ustedes entren también en eso vamos a entrar todos en todo y si lográramos un consenso completo

importante para seguir impulsando las lenguas de manera razonable de manera científica y además de manera respetuosa la manera respetuosa que fue el camino que nos marcóo la ley de normalización del uso del euskera en el año mil novecientos ochenta y dos aquí defendida

en la época del lehendakari garaikoetxea

y defendida aquí por el señor maturana de mi grupo y por el señor etxenike que estaba en el gobierno y defendido dejando esa parcela de fomento

y nos ha ido bien nos ha ido bien yo creo que el resultado es muy bueno eso no quiere decir que no nos hagamos más preguntas las preguntas son siempre saludables

contemporáneas y con capacidad de ser comprehensivas es decir de asumir también otras perspectivas de análisis importan para dar respuesta también a las necesidades actuales por lo tanto euskera sí con el fomento con impulso

euskera en la escuela pero castellano también el castellano no se aprende en la calle

ha de formalizarse como lengua que es de cultura y educación y una lengua extranjera a usted le gusta más el francés y me parece bien hoy en día la mayor parte de los centros están optando por el inglés démosle impulso a esto y vayamos a buscar más acuerdos entre nosotros nada más y muchas gracias